gracias presidenta como ustedes habrán comprobado yo no me dirijo nunca a los representantes políticos de eta aquí sentados

yo no les pido nada a los representantes

yo me dirijo siempre a los demócratas creo que

que nos dirijamos a ellos para pedirles que condenen a eta o que pidan la disolución incondicional y definitiva de eta no lo van a hacer

sino lo que seamos capaces de hacer los demócratas aquí sentados los cincuenta y cuatro parlamentarios demócratas lo que seamos capaces de hacer para conseguir la derrota

expreso a los cincuenta y cuatro parlamentarios demócratas que se sientan en este parlamento para defender juntos la democracia

que no lo son quiero hacer un llamamiento a los cincuenta y cuatro parlamentarios demócratas que se sientan en este parlamento para hacerles el vacío para

de eta mientras sigan sin condenar la historia criminal de eta eh bildu ha vuelto a insultar otra vez hoy aquí en este parlamento a la sociedad democrática eh bildu ha vuelto a insultar a las víctimas del terrorismo

eh bildu ha vuelto a justificar a eta hoy eh bildu ha hecho otra vez un nuevo ejercicio de cinismo

hoy eh bildu ha vuelto a demostrar que su legalización fue un gravísimo error y hoy eh bildu ha vuelto a demostrar qué representa

un servidor como demócrata lo que quiere hacer es un llamamiento expreso a los demócratas para que podamos defender juntos

para que podamos defender juntos las instituciones democráticas para que podamos defender todos juntos los demócratas la legalidad vigente el estado de derecho en definitiva la libertad frente a los representantes políticos de eta

hoy eh bildu ha vuelto a negarse a condenar a eta a exigir su disolución definitiva e incondicional ha vuelto a defender los postulados

nosotros como decía no emplazamos a eh bildu a nada nosotros emplazamos pedimos a los demócratas que defendamos juntos la democracia frente a quienes no son demócratas

upyd a hablar y a dialogar con los demócratas para que podamos poner sobre la mesa las mejores políticas para conseguir

en eso se van a basar nuestras propuestas de resolución vamos a presentar nueve propuestas de resolución que recogerán

de mi intervención inicial y pido a los cincuenta y cuatro demócratas que se sientan en este parlamento a que las lean detenidamente y puedan votar a favor de todas y cada una de ellas porque son perfectamente asumibles para los cincuenta y cuatro parlamentarios demócratas que se sientan en esta

pedir que este parlamento nuevamente condene a eta y su historia criminal y renueve su firme compromiso en lograr la disolución incondicional y definitiva de la banda terrorista nosotros vamos a proponer que este parlamento

en atender a las víctimas del terrorismo como merecen nosotros vamos a seguir defendiendo la necesidad de resolver todos y cada uno de los crímenes cometidos

y vamos a proponer instar al gobierno vasco y al gobierno de españa a que lleven a cabo todas aquellas actuaciones que sean necesarias para promover y lograr

de estos crímenes nosotros vamos a proponer instar al gobierno de españa a que obligue al cumplimiento íntegro de las penas por parte de los presos terroristas de tal forma que ninguno de ellos pueda acceder

o plan de reinserción sin haber pedido públicamente perdón haber condenado a eta y su historia criminal haberse arrepentido de los crímenes cometidos

con la justicia vamos a proponer instar al fiscal general del estado a cumplir escrupulosamente su compromiso con las víctimas del terrorismo en una carta que remitió a covite hace unos meses en la que manifestaba

y que se impulsarán las actuaciones necesarias para que tales hechos tengan la respuesta judicial correspondiente nosotros vamos a proponer que este parlamento inste

a que se mantenga la actual legislación en materia de política penitenciaria y vamos a proponer que este parlamento diga que sí a la doctrina parot por ser justa y por ser necesaria

inste al gobierno de españa a velar por el cumplimiento estricto de la ley y a perseguir cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico

los derechos y libertades fundamentales y la convivencia pacífica de los ciudadanos vamos a proponer que este parlamento vasco inste al gobierno de españa a que aplique la legislación y la doctrina del tribunal supremo del tribunal constitucional europeo de derechos humanos para evitar que formaciones políticas que justifican o apoyan la violencia terrorista

continuar la actividad de formaciones políticas ilegalizadas y vamos a proponer por lo tanto instar al gobierno de españa para que inste a la fiscalía para que inicie el proceso de ilegalización de bildu amaiur eh bildu porque es obvio que siguen justificando las acciones criminales de eta y no condenan la actividad criminal de eta y no exigen su disolución

hay razones suficientes para iniciar ese proceso de

piensa como upyd que eh bildu

a eta lo que procede es que voten a favor de estas iniciativas y en concreto la última que propone iniciar el proceso de ilegalización es obvio que a día de hoy eh bildu sigue justificando las acciones

lo que básicamente proponen son las medidas que los demócratas unidos deberíamos llevar a cabo para conseguir la derrota

que es lo que efectivamente sigue faltando en euskadi nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

parlamentarias el debate ha vuelto a girar por parte de los proponentes

en el conflicto el llamado conflicto vasco y si a esta cámara viniera o

este debate alguno de sus verificadores mediadores y demás

hay que recordar que vivimos en un pleno régimen de libertades hace más de treinta y cinco años hay que recordar que euskadi tiene unas cuotas de autogobierno sin parangón hay que decir que en toda europa en aquellas regiones que aspiran a tener autonomía somos

los que aspiran a tener alguna autonomía hay que recordar que aquí hace muchos años la gente elige los partidos que quiere que le gobierne elige su alcalde sus diputados generales eligen su parlamento vasco eligen el congreso eligen el senado

el conflicto vasco no tiene ningún sentido ni tiene ningún encaje en un planteamiento así el conflicto les ha servido

que decenas de miles de vascos tuvieran que dejar su tierra los últimos veinticinco años les ha servido el conflicto o el llamado conflicto suyo para hacer creer una supuesta imbatibilidad del terrorismo que se ha demostrado falsa con su conflicto

el apartamiento o aislamiento social con el conflicto o con su llamado conflicto

o los políticos del partido popular del partido socialista de otras formaciones políticas periodistas jueces empresarios

y ustedes son los que no avanzan y no han dado ni han dicho ni han hecho un solo avance mínimo en el día por eso entiendo que es necesario hacer una lectura correcta de lo que ha pasado y está pasando para que nunca

una cosa así y qué es lo que pasa como eta ha tenido que dejar de atentar

sus metas de la imposición de su dictadura en euskadi

clásicos ustedes intentan ahora conseguir esa imposición que no han conseguido matando pretenden ahora falsear la historia pretenden ahora como ha quedado

de todo lo que han hecho encima pretenden quedar de buenos y eso va a ser que no ustedes y es bueno que diga las cosas como son con su conflicto lo que quieren es eludir su culpa y avanzar hacia las metas de la banda

por eso usan de la ley solo la parte que les interesa por eso la legítima actuación del estado con la injustificable de eta por eso presentan a criminales condenados por delitos como presos políticos o por eso

por eso creen que el mundo empieza y acaba con ustedes a qué están

están a inflar su globo del conflicto están

a su matriz están a intentar que estemos todo el día en su conflicto para que al final justifiquen a eta y puedan avanzar hacia sus metas totalitarias y el partido popular está aquí

el globo del conflicto y para que se pueda garantizar la verdad la memoria y la justicia que son las bases firmes de cualquier democracia miren

con más o menos tono con más o menos palabras yo quiero que la sociedad vasca de este pleno reciba un mensaje y el mensaje es que es posible acabar con eta sin dar la razón a eta es posible y es necesario quela derrota de las pistolas le siga la derrota de sus ideas antidemocráticas y justificatorias el poder vivir en paz y libertad y esto es fundamental requiere el cuestionamiento de eta

de las leyes e instituciones que nos hemos dado por eso

decente y permanente requiere que el virus no quede latente en forma de exculpación odialización o justificación del mnlv no puede ser el futuro en paz y en libertad se niega todo lo alcanzado desde la transición por todo ello las mejores aportaciones que podríamos hacer hoy los partidos democráticos es poner las cosas en su sitio impidiendo la tergiversación

de ese totalitarismo y por eso es tan importante que hoy en las resoluciones quede clara

que no hay ninguna excusa ningún argumento ninguna justificación ningún supuesto conflicto que avale a eta y por eso también es indispensable que nunca olvidemos lo que ustedes han generado con esas víctimas y escúcheme un poco que a mí no me importan cantarle las cuarenta no soy como el de upyd escúcheme un poco mire usted

yo condeno absolutamente el asesinato de santiago brouard yo nunca

condena el asesinato de algún guardia civil de algún policía nacional de algún político de algún periodista usted es capaz de

yo sí condeno lo de brouard usted no condena a una sola víctima de eta por eso la diferencia y nosotros de este lado es que ustedes serán legales pero no son demócratas ni son decentes porque a mí me parece fatal lo de brouard y usted no le parece mal que le hayan quitado la vida a un guardia civil y eso vale

se busca o trae aquí mire aquí no hay ningún problema con un respaldo social o político

nadie respalda al gal ni la tortura ni nada parecido pero es que ustedes aquí siguen respaldando el terrorismo

pero es que ustedes en euskadi hacen y han hecho manifestaciones a favor de eta por lo tanto es el problema principal que hay

en este pleno lo han dejado muy claro no han reconocido su culpa no han mostrado

piden pasos a los demás piden pasos a los gobiernos democráticos piden pasos a las víctimas piden pasos a la parte de la sociedad que no ha atentado contra nadie qué paso tengo que dar yo que me he limitado a no tomarme nunca la justicia con su mano después de estar

yo que me he limitado a respetar lo que votaban los vascos en las urnas yo que nunca he levantado la mano contra nadie

no tendrán que darlos ustedes que son quienes no han respetado ni mi vida ni la libertad ni la tranquilidad de miles de vascos

que usted también se centre en sus planteamientos

no son aquellos como usted o como yo que siempre hemos respetado

aquí no se trata de que usted y yo subamos al monte a por ellos

a todos los demás por eso no olvide que el avance es el cuestionamiento del terrorismo

es que no cree ninguna duda de que lo que hicieron estuvo mal no el avance y el paso y la esperanza es que no se justifique ni legitime su actuación para que nadie la pueda

la mejor vacuna que podemos dar a esta sociedad vasca y a las próximas generaciones es no dejar latente ese virus de la amenaza es que no quede ninguna justificación por eso ese es el avance y por eso esa es la esperanza y yo tengo que decirles

y que el partido popular sí confía en avanzar y que el partido popular va a seguir haciendo

y no vamos a dejar de poner las cosas en su sitio por ninguna otra cosa en el partido popular tenemos esperanza cierta

con tenacidad con inteligencia y con claridad no olviden

esta cámara que cuando poco de aquí muy pocos

confiaban en que la ley y la policía acabaría con los comandos nosotros sí lo creíamos muchos que están aquí y muchos partidos políticos muy importantes siempre pensaron que

ahora cuando también puede haber gente y en algunos foros

de esos comandos nosotros los populares creemos que se puede y que se debe

porque la sociedad vasca y el conjunto de la española no solo necesita sino que se lo merece eskerrik asko

la solución para construir el futuro juntos sobre bases sólidas no es la confianza la confianza puede contribuir a que

lo que puede contribuir a que construyamos el futuro juntos sin equivocarnos

éticas y democráticas que compartamos de respeto a las reglas de juego a la pluralidad eso es lo que permite en democracia

y yo estoy de acuerdo con usted en que es imprescindible buscar el diálogo los acuerdos para temas tan importantes como

firmeza democrática también comparto con usted que sobre estas cuestiones sería bueno que siempre primara lo que nos une a lo que nos separa y también comparto que este parlamento tiene que cuidar que no se dé una imagen de ruido

pero para eso también hay que cumplir los reglamentos del propio parlamento para evitarlo y

ustedes son hijos de su historia y ustedes tienen una historia lo quieran o no vinculada a eta

lo que tienen que hacer es enterrar definitivamente el cadáver y mire referidos al marco político

los ciudadanos y ciudadanas de euskadi nos dotamos del marco jurídico que consideramos más adecuado por mayoría por una amplia mayoría yo acepto que ustedes

pero esa fue la decisión que adoptó la sociedad vasca no fue una imposición de nadie fue una decisión libre y democráticamente aceptada en las urnas

el gran problema de ustedes es que siempre confunden su representación lo que representan en euskadi con esa pretensión de querer representar al conjunto de la ciudadanía o como ustedes llaman al pueblo vasco y cuanto antes reconozcan

representan solo a una parte minoritaria de la sociedad vasca y están aquí porque seguramente por táctica y no por comisión aceptaron acogerse a la legalidad

nos hubiera gustado que lo hubieran hecho por convicciones éticas y profundas pero en todo caso casi siempre la democracia hace demócratas pero ustedes que se comprometieron a respetar las reglas de juego y la legalidad

de los estatutos de su partido y con las decisiones de los tribunales sobre su coalición tienen que seguir no solo respetando esas reglas sino asumir en su práctica diaria con profundidad y con convicción

que regulan nuestra sociedad y mire decía usted que ustedes han hecho aquí

reléanselo y revísenlo porque seguramente si lo hacen

para ustedes y desde luego

que hay principios éticos y democráticos que son básicos para trabajar juntos y para construir el futuro y mire sobre la responsabilidad desde unos y de otros los socialistas vascos no somos responsables

de marzo en vitoria no somos responsables de

pero hablemos con claridad los socialistas condenamos repudiamos rechazamos

los socialistas condenamos rechazamos y repudiamos

y contrastadas eso es lo que nos diferencia con ustedes pero en todo caso le emplazo una vez más

y diga usted lo mismo diga que usted también rechaza repudia no comparte

la extorsión el chantaje que cometió la banda terrorista eta

porque si no su futuro inevitablemente estará lastrado y condicionado por una banda terrorista que es eta

usted ha vuelto a querer mezclarlo todo nosotros entendemos perfectamente el sufrimiento y el dolor

como entendemos muy bien el sufrimiento y el dolor que tiene una madre un padre una esposa de un asesinado por eta

hay cosas que hay que dejar claras un terrorista de eta puede ser visitado

por su padre o por sus familiares cuando un familiar

de eta asesinado quiere visitar a su familiar solo puede estar con la lápida de una tumba por eso

recorriendo el camino que les lleve de verdad en lo diario en lo cotidiano a una práctica ética y democrática de respeto

de convivencia de respeto a las reglas de juego porque en democracia es clave fundamental es prácticamente lo básico es que regula nuestra convivencia reglas de juegos que nos hemos dado y a quien no le gustan

defiende procedimientos para cambiarlas y si ustedes hacen lo que tienen que hacer espero que a la tarde

el coraje y si quiere también la altura de miras de sumar sus votos a la única resolución política que mi grupo va a presentar

que solo tiene un objetivo que todos deberíamos compartir

y democrático que permita trabajar juntos con garantías de éxito y que no nos lleve a construir en el futuro una sociedad indecente nosotros queremos una sociedad plena de libertad

una sociedad donde se garantice la convivencia pero con reglas que regulen

baina kokatu egingo zaitut el tema de la famosa dispersión

junio del mil novecientos ochenta y siete cinco meses

iturbe atentado en hipercor veintiuno muertos cuarenta y cinco heridos

diciembre de mil novecientos ochenta y siete atentado en la casa cuartel de zaragoza once muertos

en medio congreso de hasi por cierto partido al que pertenecía santi brouard algo relevante ese verano pues congreso de hasi

aparece un encapuchado toma la reunión por supuesto no hay elección de nueva ejecutiva y se decide exactamente quiénes van a dirigir

estoy contextualizando empiezan los contactos preliminares de argel

de herri batasuna y es asesinado josu muguruza

en ese contexto cuando se produce eso atentados la crisis que late en la propia eta

y los presos en aquel momento cuatrocientos treinta y cinco el setenta y cinco por ciento estaban trescientos veinte aproximadamente en herrera de la mancha y alcalá meco y el resto unos ciento diez

en otros tres centros penitenciarios ministro enrique múgica y antonio asunción

son los presos los que cuestionando la estrategia de eta porque no soportan la presión

en herrera de la mancha y alcalá meco los que piden que se les separe separar

y la dispersión versus alejamiento es lo que decide el ministerio y lo practica durante muchísimos años

a lo que se les dictaba y se puede decir por parte de quiénes

ciento quince pasaron a tercer grado y setenta y ocho obtuvieron la libertad condicional porque provocaron un debate

sobre la resocialización reinserción o ahora reintegración

sabes o sabéis qué es lo que proclamaban

algunos portavoces de la izquierda abertzale y la hemeroteca está o sirve de testigo para ello ahora que están tan de moda la aplicación de la doctrina parot o no o su derogación pues había portavoces

a cumplir íntegramente su pena eso se dijo

y algunos que promovieron esa vía que no son los de nanclares que son anteriores desde luego estarían dispuestos

su pensamiento de los que dirigían entonces la organización también la política y de lo que piensan de los dirigentes actuales

eta amaitzeko sobre el denominado contencioso vasco conflicto político

ya hemos hablado suficientemente de eta hemos hecho hemos trazado la línea divisoria

la gobernación del estado en tanto que comparte el gobierno español en tanto que comparte afiliación y responsabilidades

y también el partido socialista es evidente que con independencia de la existencia de eta que afortunadamente desaparece

hay que inyectar voluntad vocación para que se produzca el proceso de disolución porque no hay un registro para desapuntarse hay que arbitrar un procedimiento para esa disolución sí existe un conflicto político de naturaleza política

después de la abolición foral sabino arana cuando crea el partido nacionalista vasco

pero que utiliza siempre vías políticas y democráticas para su resolución y por lo tanto lo mismo que esa definición de conflicto existe yo le propongo dos principios y tres compromisos que hubiéramos elevado a propuesta de resolución pero no lo vamos a hacer porque creemos que el suelo que tenemos que habilitar en este momento

en los próximos meses en esta cámara principio que ninguna causa

lo que implica la defensa y promoción de todos los derechos humanos así como la oposición al uso de la violencia a su amenaza defensa o legitimación segundo principio en un estado de derecho fundamentado en el pluralismo los proyectos con sustrato y con sustento democrático suficiente

es decir deben contar con vías de defensa y en su caso de materialización e incorporación al ordenamiento jurídico correspondiente y esto requiere de un desarrollo de eso que se llama principio democrático por lo tanto compromisos que ofrecemos

que los vascos y las vascas constituimos un pueblo con derecho y capacidad para decidir sobre su futuro y por lo tanto con derecho a ser consultado y a que su voluntad democráticamente expresada sea respetada

mayoritaria debe tener un valor relevante normativo relevante lo que conlleva que los actores políticos

los ajustes necesarios para dar respuesta a esa expresión clara de voluntad

compartir que ante el desacuerdo el método

se asiente en el diálogo la negociación y en los más amplios acuerdos entre las fuerzas políticas o en su defecto en el respeto al posicionamiento mayoritario de la sociedad ese es el debate que también tenemos pendiente lo dejaremos